gaur tribuna honetara natorkizue bueltan etorkinen eskubideei buruz hitz egitera el trece de julio del año dos mil quince

y del registro civil el seis de noviembre se aprueba el real decreto

reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad

de justicia que desarrolla los preceptos del real decreto estas normas introducen elementos de sustancia que modifican el procedimiento en relación a cómo se venía realizando hasta el momento lo fundamental de esta reforma en relación al proceso de obtención de la nacionalidad

la implantación de unos exámenes destinados a acreditar por un lado el conocimiento del español como lengua extranjera y por otro lado la acreditación de conocimientos constitucionales y socioculturales en la primera se exige acreditar un nivel mínimo de idioma y en la segunda consta de veinticinco preguntas de respuesta cerrada de las que se deberá contestar correctamente un mínimo de quince

el diseño y gestión de ambas pruebas queda bajo la competencia del instituto cervantes que es quien centraliza por decreto

o habilitación de otros centros para realizar los exámenes en la actualidad hay muchos centros examinadores y colaboradores del instituto cervantes pero en euskadi solo tres están habilitados para realizar estos exámenes la universidad de deusto en bilbao y en donostia con autorización

en donostia también autorizada para ambas pruebas la universidad del país vasco

solo está autorizada para hacer el examen relacionado con la adquisición de castellano según la ley de extranjería ley que vaya por delante no nos gusta

promoviendo la participación de las personas migrantes en los términos previstos

es por eso que hoy traemos a este parlamento esta proposición para conseguir que también en euskadi las personas que quieren acceder a la nacionalidad puedan hacerlo
en primer lugar planteamos que se pongan en marcha a través del registro civil un servicio público y gratuito de asesoría para las personas migrantes mesedez isiltasuna jarraitu

sabemos que desde el cierre de heldu y la puesta en marcha de aholku sarea hay una deficiencia importante en la atención a las personas en esta materia porque solo con el teléfono de información no es suficiente pero consideramos que este elemento tiene la importancia suficiente como para para abordarlo por separado creemos que para esta petición

la información sobre la nacionalidad para empezar es un elemento positivo

queda sujeta a criterio de cada centro así podemos ver por ejemplo que en la universidad de deusto el coste de realización de esta prueba es de ciento veinticuatro euros si además quieres hacer un curso que te ayude a preparar el examen de cinco días cuesta

ha quedado fundamentalmente en manos de instituciones privadas y con un coste que queda a discrecionalidad de dicho centro nosotras no ponemos en cuestión

lo que sí ponemos en tela de juicio es que las instituciones públicas no estén desempeñando

que a nuestro entender le corresponde en esta materia que no olvidemos que es ejercicio de derechos y ejercicio de ciudadanía el único centro público vasco solo está habilitado para realizar uno de los dos exámenes el del idioma y en uno de los tres campos el de araba

en los tres territorios vascos y además no garantiza el derecho a acceso en condiciones de igualdad y oportunidad a las personas residentes puesto que este examen se realiza solo

que cambiar pero no solo es eso en nuestra opinión y sin ánimo de infantilizar o dudar de las capacidades de nadie lo exigido en estas pruebas abarca contenidos complejos y como cualquier prueba de evaluación

y una técnica específica para ser completada en tiempo y forma hay personas que desde luego están habituadas a preparar este tipo de pruebas y quien no

pudieran intentar aprobarlo en nuestra opinión es deber de las administraciones públicas

estas oportunidades para potenciar que nuestras vecinas y vecinos de origen extranjero accedan a sus derechos en un trámite que tal y como planteamos en el punto último de la proposición precisa de una revisión porque tal y como está planteado nos parece injusto y fuera de lugar porque en nuestra opinión el acceso a la nacionalidad

lo que realmente implica en el día a día de las personas es ser parte de esta sociedad es poder ejercer en igualdad de derechos y no solo una cuestión identitaria o no solo en eso entiendo que debamos centrarnos hoy en ese sentido celebramos el acuerdo

porque planteamos por un lado estudiar la posibilidad de que las escuelas permanentes de personas adultas realicen cursos de formación y por otro lado que la universidad la upv garantice la puesta en marcha de una oferta pública homogénea y suficiente además de accesible realizar estos exámenes porque desde luego es fundamental centrarnos en buscar una solución a las necesidades de esas personas que también son nuestros vecinos

punto de nuestro acuerdo instamos al gobierno del estado también a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en lo que la propia orden ministerial establece en materia de accesibilidad

la solicitud de dispensa cito textual de personas que no sepan leer o escribir o tengan dificultades de aprendizaje

o protocolos claros para presentar esta solicitud o certificar por ejemplo el analfabetismo cuando se realiza

para cómo acceder la respuesta en concreto en euskadi es que hay que hablar con el instituto cervantes y el instituto cervantes te habla te manda a hablar con el ministerio y el ministerio te vuelve a hablar

vamos peloteando a las personas sin que la normativa que está para cumplirse se cumpla

por la vía de la práctica algo que se pueda ejercer en el punto quinto de este acuerdo instamos al estado a revisar este trámite

miembros de este acuerdo lo hará por una diferente y por eso lo hemos puesto en una forma más genérica las nuestras desde luego son que entendemos que este nuevo trámite esta exigencia de hacer exámenes son dificultades o cuestiones que pretenden o cuanto menos parece que pretendan

a la normalización y al acceso a los derechos de personas que ya están asentadas entre nosotras desde hace en la mayoría de los casos diez años

jurídico que tiene una doble vertiente por un lado es un derecho fundamental y por otro lado permite disfrutar de otros derechos y entendemos que se le puede imponer también como es obvio el cumplimiento de obligaciones

de obstáculos sino que tenemos que trabajar porque sea un camino accesible

una integración que por otro lado ya está demostrada durante el procedimiento porque también te obligan a cumplir un tiempo de residencia

de cinco dos o un año para algunos colectivos concretos

la renovación de los permisos de residencia también implica tener medios de vida suficientes tampoco entendemos este nuevo procedimiento porque creemos que la dificultad y la arbitrariedad con la que se evalúa la integración sociocultural no puede pasar por un examen

también lo hagan desde luego hay preguntas complejas y se pueden tener dificultades no solo por desconocimiento también porque esta prueba a nuestro entender no recoge ni de lejos

pluralidad social cultural y lingüística en la que vivimos en los territorios del estado por último pero a nuestro entender

porque esto afecta a las personas más vulnerables aprobar este examen es solo un problema para una parte muy concreta de la población migrada residente en el estado para la que tiene medios de vida suficientes la que tiene un nivel socio económico sociocultural medio alto las que ha podido dedicarse a estudiar antes de ponerse a trabajar

pero han tenido facilidades desde luego sacar esta prueba no va a ser un problema pero qué pasa con las más débiles o mejor dicho con las que han tenido peores oportunidades

por ejemplo en el top manta cuando el mercado de trabajo les expulsa qué pasa con las víctimas de trata que

y cuya integración va en tiempos y ritmos y necesidades distintas qué pasa con quienes salieron como niños o niñas y no aprendieron bien a leer pero llevan trabajando desde que llegaron qué pasa con quienes tuvieron que elegir entre

qué pasa con todas ellas qué pasa con las que duermen en la calle que no van a poder acceder porque no van a poder sacar este examen nosotras entendemos que hay múltiples perfiles que pueden cumplir el resto de requisitos de acceso a la nacionalidad perfiles que son muchos

ejemplos de buena vecindad en esta tierra hombres y mujeres que son tan parte de euskadi como ustedes o como yo

a los que se les impone una prueba difícilmente superable para eso traemos esta propuesta para eso celebramos este acuerdo y sí para eso también

lo digo antes de que me lo vengan a decir ustedes porque creo que admitir estas cosas es importante nos hubiera desde luego gustado llegar a un acuerdo de máximos

pero también somos personas que cumplimos la ley y que lo que sí tenemos como prioridad es buscar

más a mano el ejercicio de derechos que a veces parece casi un esfuerzo cuando debería ser algo obvio de cumplir eso sí

van a abstenerse sacamos adelante un buen acuerdo que va a mejorar la calidad de vida de muchas personas y su capacidad de ejercer este derecho pero sabemos y tenemos claro

sabemos y tenemos claro que el camino para buscar un ejercicio de derechos en igualdad de condiciones para todas las vecinas y vecinos de euskadi tiene aún mucho recorrido por hacer tenemos aún
mucho trabajo por hacer eskerrik asko eskerrik asko guanche andrea

que faciliten la realización del trámite de nacionalidad a personas inmigrantes en euskadi cuando

nos centramos en los dos puntos en los que constaba la resolución que traían para votación a este pleno un primer punto que solicitaba la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento y formación sobra requisitos y procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por la población migrante y un segundo punto

a reformar el procedimiento de acceso a la nacionalidad ciertamente la regulación sobre la obtención de la nacionalidad es una competencia que no reside en este parlamento sino que está residenciada y lo conocemos todos en el congreso de los diputados donde todos los grupos aquí presentes también tenemos representación y donde igual

esta iniciativa yo he revisado el diario del congreso se ha llevado

con relación a lo que aquí se ha manifestado y serán ellos quienes tengan que hacerlo porque fue allí

en materia de nacionalidad por cierto por enmienda y sin debate incorporando

siempre ha habido plazos o diferentes tiempos de residencia pero lo que se incorporó como nuevo fue este examen

consideramos que resulta injusto en tanto puede impedir el acceso a personas que no alcancen un determinado nivel cultural y que también es ciertamente arbitrario porque no valora

nosotros creemos desde los socialistas creemos que el acceso a la nacionalidad debe ser visto como un corolario en el proceso de integración de las personas extranjeras en españa

por ello compartimos con los proponentes y por ello hemos llegado a una transaccional la necesidad de una reforma de la nacionalidad por residencia desde el consenso y el acuerdo entre todos que incorpore una reducción de los plazos máximos establecidos actualmente

más allá del resultado de un examen como elemento preminente a la hora de evaluar las condiciones o los requisitos de acceso

de votación que nos la respalde tendrán que realizar nuestros compañeros en el congreso de los diputados por ello en el punto final de nuestra enmienda esa que ha relacionado la portavoz de podemos

por otro lado los socialistas creemos y hemos defendido en esta tribuna no hace demasiado tiempo que el registro civil

ha de ser un servicio público y gratuito en contra de lo que propugnan y pretenden otras opciones políticas que también se sientan en este arco parlamentario y creemos que es desde este servicio público del registro civil desde donde se debe continuar realizando la labor de información y asesoramiento a las personas migrantes en lo relativo a los requisitos y trámites que son necesarios por ello esta es la primera manifestación

en el primero de los puntos de la enmienda transaccional que hemos pactado con el grupo proponente con elkarrekin podemos y con el partido nacionalista vasco

y siendo conscientes de la habilitación que el gobierno le ha otorgado al instituto cervantes para la realización de los exámenes también hay que tener en cuenta que el instituto cervantes

que les ha costado realizar la prueba yo también he hecho la prueba esta misma semana sin acudir a ese manual y no me ha costado superar la prueba saben que sí se puede con quince respuestas de veinticinco se obtiene

muy obvias y otras eran lógicamente de conocimientos con respecto a la organización de nuestro estado

pertenecer por tanto con un manual de noventa y nueve páginas exclusivamente que lo tenemos además en acceso libre por internet no creo que tampoco sea tan difícil y que tengamos que centrar en eso lo que tiene que ser es que

eso lo que debe o lo que tiene que dar un proceso de integración

porque sí es cierto que este examen lo que impide y ese temario y el tener una referencias impide que los encargados del registro que en su momento

sin estar sometidos a ninguna consideración y encontramos y por eso se tuvieron que solventar en vía jurisdiccional muchas de las cuestiones peregrinas que los encargados del registro consultaban o preguntaban para otorgar o no la nacionalidad

lo realizaban por ello hemos introducido dos puntos que ha explicado muy bien la portavoz de elkarrekin podemos uno al gobierno vasco para que en el contexto de esas políticas de integración y de convivencia

y por otro lado la universidad pública vasca a que se inscriba a los tres territorios históricos como centro colaborador porque esto extenderá

en el campus de araba lo realiza la universidad pública creemos que una ampliación de esta oferta facilita

en cada territorio a los migrantes que residen en nuestra comunidad

desde aquí es mejor que se los hagamos también saber allí mismo para que se utilicen herramientas

para la obtención de los certificados de los conocimientos que les exigen en este momento para poder hacerse nacionales

de la utilización de elementos que garanticen la accesibilidad a la información de que esta sea suficiente clara manejable

hemos tenido ocasión de debatir y de exponer en varios plenos

de esta propuesta así como por el representante del pnv el señor ramírez para lograr un acuerdo y no tenga usted ningún problema en que para llegar a acuerdos se dejan pelos en la gatera

y otros sabrán por qué no han querido entrar en este acuerdo que como yo había dicho esta mañana en mi primera intervención es lo que se nos debe exigir a los que nos dedicamos

un gobierno lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra obligación de hacer propuestas y llegar a acuerdos que se trasladen a la vida de los ciudadanos y si ahí tenemos que dejar posturas maximalistas partidistas de cada uno de nosotros
un acuerdo que llegue o facilite la labor de este colectivo pues bienvenido sea el acuerdo sin complejos eskerrik asko

nos felicitamos por el acuerdo que hemos tenido y yo simplemente voy a matizar dos

de podemos usted señora guanche ha pasado muy rápidamente y casi casi sin hacer hincapié en la red que tiene el gobierno vasco aholku sarea que es del departamento de empleo y políticas sociales para informar y para asesorar en todo tipo de asuntos a la población inmigrante yo voy a traerme un poquito porque creo que su afirmación su primer punto de la pnl original en la que solicitaba al gobierno vasco crear

me parece que no es correcto ustedes siempre están denunciando las presuntas duplicidades de la administración y creo que aquí están incurriendo en una de ellas por lo que le he dicho antes usted ha pasado muy por encima de este servicio y le voy a recordar simplemente con datos para que sepamos todos de qué hablamos

que conlleva la colaboración público privada el gobierno vasco en tema inmigración

que tenía que hacerlo simplemente desde el sector público y siempre se ha apoyado en el sector privado en el sector privado no en el sector privado de las empresas privadas sino

y la colaboración de esta red de este servicio del gobierno vasco de empleo

con cite con kosmopolis y con cáritas y en gipuzkoa con la cruz roja

nueve entidades del tercer sector que están operando en todo el territorio y se dedican no solo al servicio jurídico que también está incluido porque hay un convenio como todos sabemos

dedican a dar información en general de asesoría a cualquier tipo de problemas en los inmigrantes el año pasado

no sé porque no especifica tanto cuántas eran en relación con este examen pero sí hubo cerca de ocho mil inmigrantes que fueron atendidos perfectamente bien por este servicio

y luego el servicio hizo un número de informaciones de sesiones con veintisiete mil seiscientos noventa personas es decir que desde el punto de vista de la información de qué tiene que hacer inmigrante para obtener el examen creo que el gobierno vasco tiene los medios suficientes otra cosa

el cervantes lo tiene todo online en la página web con lo cual

al inmigrante se le puede dar la dirección online de cervantes y se le puede aconsejar pero mucho más no porque no hay nada tangible cervantes

este servicio también para que veamos que la colaboración de la que he hablado yo ahora de las entidades del tercer sector

no debería crear un servicio nuevo porque ya está pagando una cantidad importante en este concepto por ejemplo la cruz roja de euskadi doscientos veintiuno mil euros anuales cear euskadi veinte mil euros anuales kosmopolis treinta mil euros anuales cite cincuenta y siete mil euros al año cáritas de bilbao veintisiete mil euros

arrazakeria gipuzkoa veinticinco mil euros es decir el gobierno vasco colabora con un presupuesto

para que estas entidades también colaboren yo creo que

yo creo que estaríamos todos muchos más tranquilos sabiendo que no solo hay una oficina pública del gobierno vasco sino que también

que también están evidentemente en la primera línea y también están para eso para informar de cómo un inmigrante puede obtener la nacionalidad

con cariño corregirla y la segunda también es otra en la cual usted decía algo así como que se le pedía al gobierno vasco gratuidad

la gratuidad tendrá que darle el que cobre y todos sabemos que el que cobra estos cursos es el cervantes que luego da un tercio de la matrícula a las entidades colaboradoras es decir yo no veo al gobierno vasco subvencionando a ningún inmigrante para que el inmigrante pague trescientos euros a cervantes y para que se quede el dinero el cervantes es decir habría que instar por eso digo el defecto de forma

cervantes a esa gratuidad o a que haga una especie de subvención

no tiene nada que ver en este examen que evidentemente solo está

de los exámenes yo le voy a leer quince líneas que son un poco el resumen que hace la universidad de deusto que yo creo que es la que más más o menos examina

que los problemas más de información son de cuál ha sido el mecanismo que el cervantes ha puesto en marcha para estos exámenes

lo cual plantea una dificultad real muchos candidatos no disponen tarjeta de crédito para realizar el pago se pierden en la web al realizar la matrícula por falta de costumbre o por no disponer de ordenador o de internet la comunicación con los candidatos se realiza por correo electrónico los candidatos no reciben resguardo alguno de su matriculación en papel

este hecho plantea dificultades a muchos candidatos los cuales carecen de cuenta de correo en los juzgados del país vasco se remiten las personas solicitantes de nacionalidad española al centro examinador para que solicite la información necesaria no se le facilita dicha información también

y por último los candidatos y candidatas a menudo pertenecen a colectivos en situación desfavorecida

acuciados por los plazos de presentación de su documentación para realizar los trámites necesarios pese a todo el resumen del año pasado es que se presentaron para el primer examen el de conocimientos geográficos e históricos

se presentaron más de quinientos inmigrantes para los exámenes en resumen yo creo que no hace falta crear un servicio público nuevo creo que está completamente creado creo que está completamente bien cubierto por las entidades del tercer sector y también por el gobierno vasco y lo que decía también antes si pedimos gratuidad que todos somos libre de pedirlo pues tenemos que pedírselo al cervantes no

cuando llegó al grupo popular esta iniciativa de elkarrekin podemos

los dos puntos fundamentales después de una justificación de motivos en los que se veía una crítica velada al sistema de adquisición de la nacionalidad

y por otro lado para modificar el sistema de adquisición de la nacionalidad es decir modificar

la regulación del registro civil incluso quién sabe si hasta la constitución para ver quiénes pueden acceder efectivamente a la nacionalidad española

por criterios de eficacia y eficiencia entendemos que no es necesario crear un servicio

nuevo y pagarlo desde las arcas públicas que bastantes servicios tiene que sostener con los presupuestos este gobierno digo que es crear uno nuevo sobre lo ya existente porque es que la información concretamente la que usted se refiere en la iniciativa la información sobre cuáles son los requisitos y cuáles son los pasos que dan esa se ofrece ya desde el registro

de problema se ofrece también desde la administración periférica del estado a través de las delegaciones de extranjería luego los ciudadanos extranjeros que quieren adquirir la nacionalidad

de ayuda y de orientación a los extranjeros donde también se facilitan todos los requisitos

la nacionalidad yo debo decirle señora guanche que

nos coloca a todos en una tesitura muy difícil usted plantea una iniciativa pide una cosa y luego acabamos hablando de otra completamente diferente es decir hemos hablado de las escuelas para adultos de la upv de la realidad del registro civil cuestiones de las que usted no nos había hablado en absoluto en su iniciativa al principio

con la cuestión que he planteado pues defender las posturas y posiciones del partido

yo le alabo el gusto por mejorar la oratoria de la cámara pero por favor no sea tan exigente con todos nosotros y menos a estas horas

y hay que interpretar la iniciativa que ha tenido lejos del acuerdo con su discurso a usted lo que no le gusta es el sistema que hay para pedir la nacionalidad

díganoslo claramente nos ha venido a decir también que es que lo que no le gusta son los exámenes que hay que pasar exámenes

exámenes de conocimiento de idioma ha habido siempre y exámenes de conocimiento de cómo exactamente aquellos extranjeros que llegaban a nuestro país

a la nacionalidad española estaban integrados qué ocurría que antes había tantos exámenes como criterios tenían los responsables de cada uno de los registros civiles

objetivo que todo el mundo pase similares pruebas sobre similares materias

el dejar en manos de la interpretación de un concepto jurídico indeterminado como es la integración en el mercado de trabajo la integración en la sociedad la integración en el entorno familiar la integración en nuestra legislación en nuestra cultura en nuestra lengua dejar ese grado de integración en manos de tantos examinadores como responsables

sí que creaba o generaba y así lo ha demostrado la jurisprudencia unos criterios de interpretación muy

el tener un criterio objetivo una materia sobre la que examinarse no es malo

es un vínculo jurídico que establece el ciudadano respecto del estado del estado

nacionalidad lógicamente porque todos tenemos derecho a tener una nacionalidad pero eso no significa que podamos optar

para obtener esa nacionalidad ese vínculo jurídico genera derechos y deberes y yo creo que sí que es importante que quien adquiere adquiere la nacionalidad española sea consciente de cuáles son no solamente los derechos sino también las obligaciones que adquiere es evidente que los derechos son muchísimos más

porque se tramitan miles de expedientes para adquirir la nacionalidad que aquellos que se tramitan

el poseer la nacionalidad española con criterios

hombre que la ley que rige cuáles son los requisitos para obtener la nacionalidad española tenga criterios españolizantes a usted le sorprende

malo preocupante y entonces sí que estaría con la señora guanche para ir al congreso de los diputados y solicitar una modificación normativa porque algo se está haciendo mal y el que no quiera obtener la nacionalidad española que no la pida es un derecho pero no es una obligación para nadie quien viene aquí y quiere obtenerla la pide y si cumple los requisitos se le da y quien viene aquí y la tiene porque la ha adquirido anteriormente o la tiene por nacimiento y no la quiere la ley también le dice qué es lo que tiene que hacer para renunciar a ella

que reniegan de ella luego a la hora de la verdad no renuncian a la misma pero volviendo al tema de los exámenes señora guanche yo creo que los criterios objetivos son mejores

si los siguientes pasos que quiere dar son mejorar esos criterios objetivos a la hora de realizar las pruebas o como bien se ha recogido en el acuerdo que vamos a aprobar

mejorar la formación o la preparación de quienes quieren acceder y presentarse a esas pruebas en eso sí que le podremos acompañar nosotros si el paso siguiente es eliminar los exámenes volver al criterio anterior de que en cada registro civil

o modificar los requisitos de que no es necesaria la residencia legal permanente por uno dos
cinco o diez años ahí no nos va a encontrar muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

bueno muy rápido el objetivo que teníamos cuando hacíamos esta propuesta

cambiar mucho todas estamos aprendiendo creo que el sistema de las mociones es bastante peor y más estresante que mis proposiciones

que a día de hoy sí o sí tienen que hacer estos exámenes para hacer

más garantista y más accesible y yo creo que en eso con este acuerdo

y lo hemos cumplido se ve o se entrevé un rechazo a los exámenes lo digo creo que lo había dicho abiertamente en el discurso inicial pero si no por si acaso yo me reafirmo rechazo el procedimiento de los exámenes coincido con lo que han dicho varias personas en este atril

va más allá de un conocimiento concreto y que se pueda demostrar mediante un examen noventa y nueve páginas es verdad señora castelo que no es demasiado y es verdad que usted siendo abogada

pero yo que he trabajado con personas extranjeras que están camino al trámite de la nacionalidad les puedo

no es nada sencillo para tantas personas como puede serlo para otras tantas y he dicho al inicio que huyendo de paternalismos o de querer

no pueda lo que creo es que la gente en la vida tenemos unas oportunidades o tenemos otras está claro que quienes estamos

más recorrido que les ha permitido hacer esto de una manera más sencilla y teniendo más oportunidades para aprobar este examen y hay otras personas pues que han tenido menos

tenemos que tener en cuenta que todas puedan acceder las que hemos tenido más y las que han tenido menos

he pasado por encima no sé si no lo he explicado muy bien porque he dicho que creo que es un tema de enjundia suficiente como abordarlo en un punto a parte

he derivado a muchas personas a aholku sarean afirmo sin ningún tipo de

heldu funcionaba mejor funcionaba mucho mejor porque las entrevistas personales siempre funcionan mejor porque no se le olvide a usted que aholku sarean tiene todos estos convenios con todas estas entidades pero el paso previo para acceder

para intentar resolver el trámite telefónicamente cosa que casi nunca pasa y que lo que termina pasando es que la gente va a las entidades que tiene de referencia que de facto las tiene de referencia

que son compañeras y compañeros que desarrollan un trabajo magnífico digo magnífico pero creo que para ahorrarnos quinientos mil euros de presupuesto podríamos volver a un servicio de tú a tú que funcionaba excelentemente y que creo que todas las entidades que tienen que ver con el trabajo de personas migrantes incluso muchas de las que prestan aholku sarean

la vuelta a un servicio como este respecto a lo de los defectos de forma en cuanto a quién le pedimos la gratuidad asumo que puedo haber cometido

y la intención repito era que desde el gobierno vasco se garantice la prestación de un servicio público y gratuito hablando con usted durante la negociación ya me informó que a quien había que pedírselo era a la upv de manera específica

así hemos corregido añadiendo que las escuelas permanentes de adultos que son elementos con

puedan complementar esto con la formación también he dicho que no cuestionaba cuáles eran las intenciones o la buena voluntad de la universidad de deusto o de cualquiera de creo que es fedele el nombre de la otra delegación guipuzcoana que

es que no haya una oferta directamente pública desde luego que cuestiono que el instituto cervantes cobre por esto y no lo pueda hacer gratis

reclamaciones y señor ruiz de arbulo una última cosa

arbitrarios no son el camino a recuperar desde luego que no yo he estado presente en exámenes de nacionalidad y he visto las entrevistas que se tenían en el pasado

digo en lo personal y creo que la de elkarrekin podemos en general sería eliminar estos exámenes porque como hemos dicho antes no nos parecen justos pero sí que

que la importancia de los trámites de nacionalidad como he dicho durante mi discurso inicial no tienen que ver con la identidad o con el sentir de cada cual tienen que ver con que

es perder la vida haciendo papeles es estar constantemente asustada porque vas a preguntar al registro civil y lo que te dicen no lo entiendes

porque te pueden pasar un montón de cosas que se supone que los trámites que facilitan la vida a las personas

y a veces lo que hacen es ponerles piedras en el camino desde luego que yo apuesto por un sistema en el que el acceso a los derechos vinculado o no con la nacionalidad eso lo podremos debatir

por simplificar y dejar solamente a manos de un examen concreto

en esta nuestra comunidad venga eskerrik asko eskerrik asko

lo que quería decir también era que no se tomaban en cuenta las diferentes identidades naciones maneras de ser sociedades que se podían encontrar en esta

y bueno que me parecía eso también por supuesto que las personas que los piden que lo piden con esa necesidad identitaria pues no nos vamos a meter ahí pero que como comentaba

la mayoría edo muchísimas personas que lo piden lo hacen por los problemas que le crea el vivir en un estado que tiene la ley de extranjería que tiene

y voy a decir bueno voy a hablar de un caso concreto que mi madre si me escucha me va a machacar pero ella es francesa y nunca ha querido tener la nacionalidad española porque ella

la nacionalidad y todos los problemas que le ha supuesto la ley de extranjería el no poder votar el no poder participar en diferentes bueno de diferentes maneras etcétera

en casa y bueno pues me parece que tener en cuenta las bai

es curioso pero a veces cuando nos venimos a una tribuna exageramos un poco la situación señor ruiz de argulo hombre

la propuesta original y la transaccional hay una cierta diferencia pero también es cierto que no se la ha encontrado usted de sorpresa hoy aquí a la mañana porque con usted también hemos estado hablando

que bueno no es fácil transaccionar cuando se quieren modificar determinadas cosas y cuando hay distintas sensibilidades que introducir dentro de una misma propuesta

por dónde iba si va un poco con respecto a la modificación de o sea con respecto a la situación que tenemos en este momento con la población migrante la ley de extranjería y las diferentes posturas que tenemos nuestros grupos los distintos partidos o los distintos grupos parlamentarios

hombre ustedes también acaban de registrar el día creo que es diecisiete de marzo de este año una proposición de ley en el congreso de los diputados para mejorar y así lo han titulado

que los del entorno se abre la posibilidad más allá del tema de exámenes a poder probar también ese proceso de integración de otras fórmulas nosotros lo que décimos es que sabe perfectamente que el partido socialista rechaza la ley de extranjería no compartimos esa visión que tiene usted yo no he venido hoy aquí de hablar de la ley de extranjería sino de un procedimiento concreto el de nacionalidad y que es cierto la nacionalidad opta a ello no se le obliga a ello entonces si alguien quiere quedarse con una nacionalidad francesa pues tendrá que ser con las condiciones que se ponen en esa situación

somos nacionales de este país pues lógicamente no tenemos limitaciones ni se nos aplica la ley de extranjería y es cierto que la ley de extranjería tendríamos para debatir pero no es

y es quien además de hablar puede modificarla yo lo que quiero dejar claro hoy aquí es que el acuerdo que es lo importante a lo que hemos llegado y lo que pretende exclusivamente es que

de las personas migrantes llegan al registro civil porque saben que es allí donde se tramita su expediente y hay margen de mejora hay margen de mejora y la información que se les da y en una coordinación de los distintos sistemas servicios organizaciones que trabajan

informarles no solo estas cuestiones sino también de otras yo creo que hay margen de mejora y que es importante que este parlamento diga que lo hay y que vamos a ofrecer también ese servicio de información y que vamos a poner los medios adecuados para que podamos ayudar en la realización de estos trámites y lo demás que decíamos es que se pueda intentar estudiar la posibilidad para facilitar la preparación a este colectivo de esos exámenes en tanto en cuanto tienen que estar y que es una opción para un requisito una condición

que se tengan más centros porque más centros son más oportunidades y más cercanía eso significa menor coste que la información sea accesible y en eso estamos todos de acuerdo y en que revisemos la normativa vigente lógicamente cada uno después defenderá allí donde la tiene que defender que es en el congreso de los diputados en qué sentido la quiere modificar el partido popular en su iniciativa se ve en qué sentido quiere hacerlo el partido socialista

elkarrekin podemos eh bildu y el partido nacionalista vasco pero aquí lo importante bajo mi punto de vista es conseguir entre los grupos que pertenecemos a este arco parlamentario llegar a acuerdos que se puedan trasladar en alguna manera a este colectivo y que podamos facilitar aunque sea en un pasito pequeño que luego se podrá dar otro y luego otro pero siempre caminando hacia adelante cuestiones

a ellos su situación porque para eso nos han elegido y en eso nos tenemos que esforzar eskerrik asko castelo

puedo votar en las elecciones francesas del próximo domingo ni en las que hay en otoño en alemania es decir cada nacional tiene derecho a votar en las elecciones legislativas y a elecciones de los órganos de gobierno de su propio país y eso es muy libre cada uno de optar a la nacionalidad cuando cumpla los requisitos señora guanche

arbitrarios son cuando se saltan la ley en función de capricho de la voluntad del que plantea el criterio lo que tenemos ahora son criterios más homogéneos

esa reforma que se ha planteado en el congreso de los diputados porque es que no podemos confundir

porque pueden tener nacionalidades comunitarias o extracomunitarias y siguen siendo ciudadanos de pleno derecho

con muchos derechos y menos obligaciones al adquirir la nacionalidad posiblemente se adquieren ya más obligaciones que los derechos que ya tenían anteriormente

porque son ciudadanos de la unión europea es la unión europea la que tiene de alguna manera que homogeneizar los sistemas de adquisición de la nacionalidad porque pueden adquirir la nacionalidad española acto seguido irse a vivir a dinamarca o irse a vivir

esa ciudadanía europea con todo lo que conlleva por eso es necesario reforzar el sistema homogeneizarlo y plantear criterios objetivos por lo tanto sí es bueno que existan exámenes el último punto del acuerdo que nosotros ya le he dicho antes que vamos a apoyar dice que

puedan acceder en condiciones de igualdad a la nacionalidad igualdad para los iguales lo que no podemos hacer es una y pretender que todos los extranjeros

puedan acceder a la nacionalidad en las mismas condiciones no es lo mismo acceder teniendo la residencia legal durante dos o diez años en función

que sepas leer y escribir o no lo sepas que son cuestiones que prevé la legislación actual y por eso tasa sistemas distintos para poder acceder a la nacionalidad o simplemente ser de un país o de otro las condiciones en las que un ciudadano ecuatoriano viene aquí no son las mismas que las de un ciudadano de tailandia

y nuestra historia y sobre todo los acuerdos internacionales que tenemos suscritos con otros países por lo tanto modificar el sistema para avanzar en homogeneizar los criterios sí
y en tratar igual los que sean iguales pero desigual a los que no lo son muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna eztabaida amaitu denez

señoras y señores parlamentarios consejero bien estamos

proposición no de ley que es de solidaridad muchas veces en este

en este parlamento nos encontramos con el análisis de propuestas de pronunciamientos sobre realidades desconocidas lejanas

con mínimos vínculos políticos históricos humanos pero hoy hablamos de algo que conocemos en esta misma cámara muchos serán además las relaciones con venezuela

y por ello la preocupación sobre la situación es especialmente cercana es especialmente emotiva podríamos decir y sobre todo hablando como lo vamos a hacer de la defensa de los derechos humanos y de la democracia y de las libertades la verdad es que poco hay que explicar

los venezolanos y las venezolanas lo están pasando realmente mal y la dictadura de maduro cada día presenta síntomas de más hostilidad a la democracia de más distancia con su gente con sus nacionales de más burla a los requerimientos

para acabar con la represión y de más odio hacia los que no piensan como los que en este momento ostentan el gobierno es decir hostilidad

conforman hoy la definiciónde una actitud institucional que cada día indigna más al mundo y a los defensores de los derechos humanos y las libertades ciudadanas

todo lo que se le ocurre al presidente maduro lleva a cabo son gestos

son gestos absurdos son gestos ilegales son gestos disparatados y es el análisis de lo que ocurre en su país y no otra cosa ninguna equiparación o ninguna comparación

ese país como está venezuela y desde luego protestar por cómo está evolucionando hacia el abismo

presentamos esta proposición no de ley hace algo más de mes y medio

y todas malas todas las cosas que han pasado desde ese hace mes y medio que presentamos esta proposición no de ley con una situación alarmante todas han sido

muertes de manifestantes todos los días represión permanente y constante paramilitares

acorralamiento de la oposición es decir un mes y medio más de agonía de un gran país con el que vuelvo a decir los vascos tenemos

familiares históricos económicos emotivos por ello la cuestión no es pacífica en venezuela esta cuestión hoy no es pacífica en venezuela pero sí

con el análisis y con la respuesta a la situación de ese país hermano

lo que yo creo que es la pulcritud de la enmienda de transacción que hemos firmado

socialista el grupo nacionalistas vascos en relación con el texto que se ha presentado a la votación en esta cámara agradezco además al señor aguirre sus buenas mareas en relación con la aportación y con

del texto y es desde luego el respeto a los derechos humanos las separación e independencia de los poderes del estado

el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas esos son los valores esenciales de la democracia ninguno de ellos está hoy vigente en venezuela

cercenando cada uno de estos principios esenciales de la democracia hasta llevar a los venezolanos y

situación que hoy viven en venezuela hay al menos más de ciento veinte presos políticos los principales líderes políticos están encarcelados o han sido inhabilitados los medios de comunicación independientes cerrados por decisión gubernativa más de

tribunal penal internacional el gobierno de venezuela ha ocupado todos los poderes del estado y se sirve de ellos para anular

dicte las leyes y las normas legislativas sin ningún control parlamentario a esta crisis política

social que arroja cifras de un país en guerra

que huir del país la violencia se ha incrementado hasta situar a venezuela como el segundo país del mundo con mayor número de homicidios

solo en el pasado año dos mil dieciséis la ocupación y usurpación de propiedades privadas

que el gobierno ha promovido durante años han terminado por destruir el tejido productivo del país provocando el desabastecimiento de alimentos y bienes de consumo diario

leche aceite pescado o simplemente papel higiénico o jabón es cada día mucho más difícil

se agrava aún más cuando se trata de conseguir medicamentos los hospitales no tienen material quirúrgico indispensable las farmacias no tienen ni los medicamentos de uso cotidiano la crisis humanitaria es de tal magnitud que las principales organizaciones internacionales llevan años denunciando la gravedad de la situación
isiltasuna mesedez y advirtiendo de las dramáticas consecuencias que están
en ese país en venezuela diferentes organismos e instituciones personalidades de relieve internacional entre ellas el propio vaticano han propiciado un dialogo entre el gobierno y la oposición con el propósito de encontrar salida a la tragedia que vive el país

ni ha habido compromisos electorales ni muestra alguna que haga pensar en una solución al contrario los hechos acaecidos

de mayor endurecimiento y represión por parte del gobierno incluido el autogolpe de estado que ya son varios por cierto y el desguace del sistema constitucional bueno con estas claves yo creo que poco más hay que decir todos lo conocemos todos lo sabemos lo hemos visto nos lo han transmitido y lo vemos a menudo por ello hemos presentado una sencilla y clara enmienda de transacción en relación con la propuesta original y en ese sentido décimos una serie de cuestiones que el parlamento vasco

incluyendo la de jon goikoetxea de origen vasco a fin de facilitar un verdadero diálogo inclusivo y efectivo que permita la reconciliación entre venezolanos algo que debiera ser de cajón y que yo supongo no se opondrá nadie en esta cámara

sus condolencias a los familiares de los fallecidos en las manifestaciones y pida investigar

estamos viendo cómo en cada manifestación se producen muchos heridos y muertes desde luego por la actuación de la represión se demanda

detraídas a la asamblea nacional y que la constitución le atribuya así como el respeto total e inmediato a los calendarios electorales previstos en la constitución

solicita al gobierno de venezuela que los organismos internacionales humanitarios del sistema de naciones unidas y regionales

el país para colaborar con las autoridades determinar el alcance de la crisis humanitaria y establecer los medios precisos para revertir la carencia de medicamentos y alimentos esenciales

la onu de naciones unidas en relación con los derechos humanos hablar en relación con esa situación que le impide trabajar de una manera efectiva

en ese país también como quinto punto se exhorta al consejo

de la unión europea sobre venezuela diseñando y planificando acciones concertadas que garanticen el respeto a los derechos humanos la restauración de una democracia real y hacer frente a la grave crisis humanitaria del país

es el apoyo a la mesa de diálogo y negociación entre el gobierno de venezuela y la oposición hemos puesto auspiciada por el vaticano por

de restauración del orden democrático sabemos que estas iniciativas también a veces también están incluso

están ahí como elementos de referencia y pide a la oea

posibilitar la vuelta de la oposición a dicha mesa ya sabemos ahora que venezuela también quiere entrar en guerra política diplomática con la oea verdaderamente demencial y contraproducente que revela una vez más el talante de ese propio gobierno y

desde luego algo que no podía faltar y que tiene que ser así es la denuncia de la reciente maniobra del de convocar una asamblea constituyente decisión que busca una vez más evitar las elecciones evitar la democracia y la expresión de ese voto democrático de los

de mínimos la que estamos planteando en relación con los derechos humanos en relación con la democracia en relación con la defensa de los procesos electorales en relación

y son cuestiones mínimas para evitar desde luego la agonía para evitar el abismo para evitar el caos vuelvo a repetir en un país
con el que los vascos tenemos tantos y tan entrañables vínculos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

por la situación económica social y política que vive la república bolivariana de venezuela y hacemos un llamado al gobierno de maduro y a la oposición venezolana

a la mesa de diálogo auspiciados por el vaticano e instancias regionales y retomen la agenda como único modo de avanzar conjuntamente

rechazamos sin excepción cualquier intento de desestabilización del orden externo o interno en venezuela hacemos nuestras

al señalar que no es el camino del unilateralismo la confrontación y la polarización mediática los que conseguirán que venezuela salga adelante

debe encontrar los caminos para salir de esta encrucijada

gracias señora presidenta consejeros señorías buenas tardes a todos y a todas es cierto se ha comentado

hay una crisis humanitaria de forma cada vez más intensa sufrido por la mayoría de venezolanos y venezolanas

y hay un aumento diario de las víctimas de esa violencia nosotros compartimos nosotras que hay un precario

no independiente y hay una deficitaria garantía del pluralismo político

lo compartimos y no nos conformamos con esta situación de emergencia democrática y humanitaria del pueblo de venezuela desde el grupo parlamentario socialista queremos expresar la solidaridad que ya se ha hecho

discurso y nuestra alarma por lo que está sucediendo y es verdad que hay una situación de violencia y es verdad que hay una situación de precariedad democrática y de vulneración de los derechos humanos no hace falta que lo reitere continúa la violencia en las calles

las sobrevivientes de la violencia de género encuentran obstáculos para acceder a la justicia hay campañas de descrédito persecución y discriminación contra periodistas

hay encarcelamiento de personas críticas con el gobierno y miembros de la oposición política hay un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad incluso trabajos forzados hay un nuevo régimen de trabajo temporal obligatorio porque las personas empleadas en el sector

a transferirse en ocasiones obligatoriamente a la producción de alimento y eso es trabajo forzado y esto no lo digo yo ni no lo dice ninguna conspiración internacional

dos mil dieciséis dos mil diecisiete sobre la situación de venezuela eso sí

diré que venezuela no es el todo ni todo es venezuela

y las vulneraciones de los derechos humanos comparto con la señora etxebarrieta que hay

muchos más países en los que esto sucede y así se ha declarado nadie se acuerda de turquía

de rusia de chechenia y una infinidad que es que a lo mejor agotaría los diez minutos en decir

de las libertades públicas de la justicia independiente y de la garantía del pluralismo y a nosotros diré que nos preocupa y nos ocupa venezuela como nos ocupa y nos preocupa arabia saudí y no hacemos ninguna

posición contraria que nos posicionemos sino que entendemos

requeriría un tratamiento mucho más amplio y mucho más sincero por parte de los grupos políticos de todos no voy a hablar de unos y de otros

establece en la enmienda transaccional porque no podemos estar de acuerdo con decisiones que entendemos que son arbitrarias y antidemocráticas

que cesen esas propuestas y que vuelva a la mesa de diálogo él también con unas condiciones adecuadas para la oposición

decisiones entre ella la de la convocatoria de la asamblea constituyente que no respeta el voto secreto y universal y la recuperación íntegra de las competencias de la asamblea nacional

que el tribunal supremo haya anulado una declaración de la propia asamblea nacional contra los derechos de las personas gays

nos preocupan todas las violaciones de los derechos en venezuela por tanto diré que no voy a poner ningún adjetivo más a lo que

y lo único que me permitirán ustedes es incidir dentro de la enmienda transaccional en esa llamada al diálogo tanto por parte

de la oposición pero lo diré porque esa misión de diálogo auspiciada por el vaticano y unasur nos parece una vía desde la reconciliación y el respeto

mutuo que puede conseguir la restauración íntegra con todas las garantías del orden democrático como socialista

fernández y torrijos con el que está haciendo la iglesia católica y el papa francisco

este trabajo y esta apuesta por la recomposición

no sentimos representados con esa tarea de solidaridad y cooperación

y con su reivindicación del diálogo y el respeto en primer lugar para abordar los conflicto y controversias entre los poderes institucionales en venezuela en segundo para abordar la reconciliación que es tarea imprescindible y en tercer lugar para conseguir

pacificación del dialogo político en venezuela

subrayan desde el señor bollain hasta el señor damborenea pasando por muchos miembros de esta cámara pero no puedo sentirme más orgullosa de haber compartido

y la palabra la política empieza siempre en la palabra las palabras conforman las ideas y cada palabra puede ser un cauce de acercamiento o una vía de rechazo

querido josé luis lo comparto no hay política en la violencia en el fanatismo en la no democracia ni en el rencor

esas son mis convicciones son nuestras convicciones de acuerdo de arriba abajo y de izquierda siempre a la izquierda con josé luis rodríguez zapatero

aquí y en venezuela gracias eskerrik asko romero

zehazki porque a mí no me parece democrático señora etxebarrieta un poder como es el tribunal supremo un poder judicial venga a capturar o a robar las competencias de un parlamento como este

y yo tengo más relaciones con venezuela que con turquía pero no me cuesta nada criticarle al presidente maduro y criticarle al presidente erdogan porque yo creo que van por un camino similar van a instalar una dictadura de facto eliminando los poderes de la democracia los poderes

usted bien conocerá definida tan bien separación de poderes venezuelako egoera politikoaz aparte

la república bolivariana de venezuela vive desde hace mucho tiempo un periodo complicado situación política pero también socioeconómica crítica

deterioro sistemático y exponencial de la democracia y descalabro de los servicios

aumento continuo del nivel de la pobreza carencia de productos sanitarios alimentarios como lo ha dicho ya el señor barrio y deriva hacia un país que ya no tiene prácticamente futuro en el año dos mil quince

el fondo monetario internacional hizo una previsión de inflación para venezuela del noventa y seis coma ocho por ciento para ese año es cierto que el fmi se confundió

porque el año terminó con un doscientos setenta y uno por ciento de inflación

en este año dos mil diecisiete los precios se van a multiplicar por ocho lo que supone

y volverán a multiplicarse por veintiuno según el fmi

en total acumulando dos mil diecisiete y dos mil dieciocho vamos a multiplicar los precios por ciento setenta y ocho y tener una inflación

en dos años y qué más da con estas cifras que el presidente maduro el pasado

si en dos días ya se lo ha comido la inflación según un estudio realizado por tres universidades la católica andrés bello la simón bolívar y la universidad central de venezuela el setenta y tres por ciento de los hogares ya están

para comprar lo que el gobierno llama la canasta alimentaria mínima hacen falta diecisiete salarios mínimos

la canasta alimentaria mínima si eso no es deriva democrática en una situación

y como los precios en bolívares dan lo mismo voy a hacer algunas equivalencias en gasolina artículos de gran consumo y gasolina gasolina que el propio nicolás maduro incrementó en febrero del año dos mil seis de un día para otro

sesenta veces de un día para otro bien pues para comprar el equivalente de dos kilos de edulcorante de sacarina hacen falta quince mil ciento noventa y tres litros de gasolina

medio kilo de café trescientos cincuenta y ocho litros de gasolina una lata de pepsi

medio kilo de galletas las más baratas doscientos treinta y ocho litros de gasolina un kilo de harina de maíz que utiliza la gente para hacer las

una latita de ciento ochenta gramos de atún setecientos treinta y nueve un desodorante doscientos litros de gasolina ya le he dicho al señor barrio no hay papel higiénico no hay

y el pasado mes de marzo venezuela fue declarada nación

la semana pasada o hace quince días mejor dicho un nuevo jet para desplazamientos personales de sesenta y cinco millónes de euros

y si esto es realmente la revolución bolivariana pues

y en venezuela falta de todo y sobra violencia y sobra corrupción lo ha dicho el señor barrio el segundo país del mundo con más homicidios por otra parte

ha obtenido dieciséis puntos sobre cien en el índice de percepción de la corrupción que publica

con esa puntuación se sitúa en el puesto ciento sesenta y seis de ciento setenta y seis países

afganistán libia sudán yemen siria corea del norte sudán y somalia beraz

sinesten dugulako queremos también denunciar el sometimiento del poder judicial al gubernamental ya desde el año pasado las detenciones

la represión desproporcionada de las manifestaciones con uso de armas de fuego

de las detenciones arbitrarias y más allá de que venezuela haya anunciado su salida

pedimos a esta organización que junto a una sur al vaticano etcétera convenza a la oposición

y que se puedan organizar rápidamente unas elecciones limpias y democráticas

llegó el día venezuela como cortina de humo una vez más cuando el pp tiene muchos casos de corrupción que tapar saca a venezuela a relucir y claro

un telón nuestro grupo decidió no presentar enmiendas a esta proposición no de ley ya que considerábamos que era una propuesta que sigue la misma estrategia que las presentadas en europa y en el congreso de hacer demagogia y sobre todo enredar y complicar

a resolver las situaciones que se están dando en venezuela además hecha a conciencia enrevesada para que prácticamente ninguno de los puntos pudiera ser apoyados venezuela sufre sin duda una grave crisis a todos los niveles una grave crisis económica primero fruto de decisiones erróneas también del gobierno pero fruto también indudable de una coyuntura económica que ha hecho que

baje hasta niveles hace muchos años no visto y también por una estrategia de la patronal con apoyo de la derecha que está ahogando la economía venezolana en venezuela es cierto que hay una polarización política y social pero hablando de polarización

un golpe en el que participó activa y decididamente una parte de la actual oposición autodenominada democrática por cierto golpe que contó con el apoyo decidido de josé maría

en palabras de el ex ministro de exteriores moratino y también aplaudido por destacados miembros del pnv como iñaki anasagasti en venezuela se dan y condenamos unos niveles de violencia tremendamente preocupantes esta es una cuestión que nos preocupa sobremanera puesto que toda diferencia política creemos que puede y debe resolverse sin

en todo caso cabría preguntarse si los grupos proponentes aceptarían en euskadi acciones violentas como las que se están viviendo en estos días en las calles de

en todo caso es imprescindible manifestar como no podía ser de otra manera nuestra condolencia a todas las víctimas familias y a sus allegados porque nunca estará justificado perder la vida siguiendo el guión que nos presentan en la enmienda transaccionada lo que existe

de carácter violento o ilegal no hay nadie encarcelado por opinar ni por participar en una manifestación y en el caso de que haya habido detenciones

y los libera exactamente eso que están diciendo que no hay en venezuela existen más de cien partidos

en el noventa por ciento de ellas no hubo ningún tipo de incidente la asamblea nacional tiene ciento doce diputados de la oposición

de las fuerzas que apoyan al gobierno extraña dictadura de hecho la derrota electoral fue admitida desde el minuto uno por parte de las fuerzas que apoyan

hay decenas y decenas de periódicos el noventa por ciento de las radios son privadas más de la mitad de los canales de televisión son privados así que no echemos leña al fuego en cuanto al diálogo

por cierto también una parte de la oposición desgraciadamente ahora mismo aislada y minoritaria por dos partidos radicales por qué no ayudamos a esa parte de la oposición a que se incorpore al diálogo por qué no hacemos eso y no echamos leña al fuego a las fuerzas de la oposición que no quieren ese diálogo un diálogo que respaldamos

y un diálogo que en palabras del papa peligroso comunista dijo que estaba sorprendido de que era la responsabilidad de la división de la oposición la que hacía que no se podían volver a sentarse en esa

el origen de la polémica hay una pelea con tres actas de diputados de la región de la amazonía que se ha demostrado entre otras cosas entre otras cosas que compraron votos solo de tres

no habría ningún cambio en la correlación de fuerzas y esa asamblea que el tribunal supremo le dijo que tenía que no reconocer a esos diputados hizo desacato al tribunal supremo imaginemos no que el congreso de los diputados o este parlamento hiciera desacato al tribunal supremo por cierto me quiero sonar que un tal oms acaba de dejar su escaño de diputado

se imaginan qué hubiera pasado si ese desacato hubiera sido por parte del congreso en cuanto a los organismos internacionales

en esta propuesta pero tiene evidentes errores porque naciones unidas parte en venezuela y venezuela toma parte de naciones unidas hay problemas pero no hay crisis humanitaria y el declarar una crisis humanitaria y no seamos ingenuos el derecho internacional humanitario justifica intervenciones extranjeras en venezuela no hay una crisis humanitaria hay muchísimos problemas de distinta índole y eso nadie lo niega

pero venezuela también aceptó el noventa y siete por ciento de las recomendaciones del consejo de derechos humanos que hizo de su último informe

está cuestionada en todo el continente y desprestigiada y creo que llamar

democráticamente creo que no es la mejor manera de llamar al diálogo en cambio y ahí estamos de acuerdo llamar a unasur y a la celac porque ya no es tiempo de ministerios de colonias y llamar a estas dos organizaciones américa latina

en que tienen que liderar ese proceso de diálogo y la referencia a la unión europea

he leído posición común he sentido vértigo de lo que estaban intentando

con estas palabras porque este error ya fue cometido por la unión europea con cuba de nada ha servido esa posición común hacia cuba comandada

ese error de posiciones comunes de la unión europea en cuanto a la propuesta

de asamblea constituyente realizada por el presidente maduro yo no sé si está la cosa tan enrevesada por la distancia o que no se han enterado bien de lo que están proponiendo

varias afirmaciones de diputados de la mesa de unidad democrática lleva

votada por todos los venezolanos y que ahora también defiende la oposición durante muchos años lo estuvo combatiendo

las constituciones votadas democráticamente el objetivo de esta asamblea constituyente y así se ha dicho es abrir un espacio de diálogo entre todos los sectores todos sin descartar ninguno de la sociedad venezolana recomponer consensos

un proceso de elecciones en los que todos los poderes públicos todos

se sometan a las urnas y no se disuelve ninguna asamblea porque la asamblea nacional aunque siga en desacato sigue funcionando y además

que las está organizando el consejo nacional electoral con voto secreto y directo para elegir a quinientos

constituyente no me sorprende desde luego que el pp y el pnv apoyen a la oposición de derechas en venezuela es legítimo

a cabo una vía para asegurar la justicia social y la solidaridad al margen de la situación de crisis que está viviendo en este momento

antes de la llegada de la revolución a venezuela había miles y miles

seguro que el señor aguirre lo conoce que no tenían derecho a voto porque ni siquiera estaban censados ni siquiera el gobierno había hecho ese esfuerzo

van a poder opinar a favor o en contra de lo que ellos consideren y es normal

responden a necesidades de la ciudadanía o del pueblo pero que aunque no le gusten

respeten porque ha sido el propio pueblo el que ha votado por ellos tanto por el gobierno como por la asamblea

para derrocar gobiernos elegidos democráticamente es curioso que al gobierno de colombia se le anime señor barrio y al gobierno de venezuela se le exija y se le condene es curioso

esta iniciativa vamos a votar en contra de ella y ratificamos nuestro respaldo al pueblo de venezuela a su ordenamiento jurídico al diálogo

para resolver las diferencias políticas nuestra solidaridad con todas las víctimas y por supuesto nuestro respaldo a la justicia social a la democracia y
a la libertad de los pueblos del mundo eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta señor martínez comenzaba su intervención claro diciendo que este alegato esta iniciativa

aquí lo que estamos viendo todos los días son cortinas de fuego cortinas de balas cortinas de pobreza y cortinas de represión eso es lo que estamos

en relación con lo que ha sido la oposición a esta iniciativa igual piensa que esas cosas igual usted se las cree igual si usted piensa que las tenemos

ha pasado a sus socios por el mundo en relación con esta cuestión

estructurado en ese sentido en relación con esa cuestión y me doy cuenta hasta qué punto puede llegar a ser importante

entiendo que tiene que haber unas dependencias que desde luego a mí se me escapan pero que desde luego no puedo compartir que tengo que denunciar y que desde luego enmascaran

que cortinas de humo su propio discurso en relación con esta cuestión y cómo que no puede apoyar ninguno de los puntos usted me ha dicho

una elaboración de una iniciativa para que no puedan ser apoyadas pero dígame que no puede apoyar ninguno de los puntos es y una lectura antes en relación con las cuestiones que incluía las exigencias de

de este parlamento transmite sus condolencias a los familiares de los fallecidos en las manifestaciones y pide investigar en profundidad esas muertes no me diga que usted no puede apoyar

que no se puede pedir la inmediata liberación de todos los presos políticos incluyendo la de

pedir la libertad del señor antonio ledesma o del señor leopoldo lópez o sea no me diga que no puede hacerlo

no me diga que no puede exhortar a la unión europea a que dé pasos algunos ya los ha hecho incipientes pero no me diga que no se puede denunciar la situación en relación con la crisis humanitaria y permitir que haya un análisis por parte de las autoridades

efectivamente a las declaraciones del alto comisionado de las naciones unidas

y desde luego lo que supone la amenaza por parte de venezuela del abandono de la oea dijo que no tiene permiso para supervisar los derechos humanos en venezuela lo ha dicho el alto comisionado de la onu de las naciones unidas el señor zeid raad al hussein lo ha dicho o sea

con venezuela es decir y los últimos pronunciamientos ahí están el pronunciamiento del parlamento europeo por amplísima mayoría el jueves veintisiete de abril el senado la semana pasada con el ochenta y siete por ciento del senado al oea ahora resulta que el señor almagro

contundentemente pues ahora está descalificado el señor

de la oea está perfectamente consolidado y está perfectamente legitimado para establecer las críticas contundentes en relación con la dictadura del señor maduro lo ha hecho y lo ha hecho así lo ha hecho con esas palabras el señor

por parte de un régimen que ha violado la constitución en todos sus principios fundamentales un fraudulento llamado a una asamblea constituyente

prisión política de sus ciudadanos ha violado la independencia del poder judicial de los derechos sociales de su pueblo que no accede a sanidad ni a alimentos vale lo dice la oea a través de su secretario general

con el asesinato impune por parte de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de ciudadanos que se manifestaban pacíficamente que eso tiene que dolerle mucho a quienes han dependido financieramente del régimen de maduro ya lo sé señor martínez es duro pero reconozca hagan una reflexión tienen una oportunidad de hacerlo en este parlamento

pero no me venga con el argumentario en relación y en el argumentario de carácter internacional supongo que la embajada o alguna persona o algún diplomático les habrá dado una serie de consignas en relación con esa cuestión

quiero acabar desde luego no ha habido más que ver los editoriales los artículos de toda la prensa internacional y española estos días

cómo debe de actuar en relación con el régimen venezolano lo hemos visto era impecable la opinión

periódicos he estado viendo una cantidad de periódicos europeos

en relación y la verdad es que no he encontrado ninguna excepción muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

es una invención no es un pronunciamiento que se haga sobre conclusiones vacías lo que yo he denunciado respecto a la situación de venezuela

internacional sobre el dos mil dieciséis dos mil diecisiete yo creo que los informes de amnistía internacional

de derechos humanos de naciones unidas como la democracia no se coge esto sí esto no

que esto lo cumplo esto no lo cumplo y esto me gusta o no me gusta

palabras mías o prometo como le guste más la información general es la que se dice y amnistía internacional habla de impunidad

y lo que supone eso para la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias amnistía internacional habla de uso excesivo de la fuerza amnistía internacional habla de defensores y defensoras de los derechos humanos

por parte de los medios de comunicación estatales y de altos cargos gubernamentales

pero está a disposición de todos y de todas habla de condiciones de reclusión con graves problemas de hacinamiento habla de detenciones y reclusiones

habla de que se encarcela a personas que se oponen políticamente al gobierno habla de desestimación de recursos contra la pena de cárcel impuesta a un preso a conciencia leopoldo lópez y hoy mismo amnistía internacional en las redes

la situación a la que se somete a leopoldo lópez en prisión dado que está

letrados amnistía internacional habla de la abuso de la policía y las fuerzas de seguridad

de la violencia contra mujeres y niñas de los derechos de lesbianas gays bisexuales transgéneros intersexuales

habla de acciones contrarias a los derechos sexuales y reproductivos de incumplimiento de disposiciones legales para garantizar y regular la consulta a los pueblos indígenas sobre cuestiones que afectan a sus medios de vida habla de la afección también al derecho a la salud de la falta de alimentos

insisto no se coge una parte o no se coge el todo lo he dicho antes venezuela no es el único país del mundo que requiere nuestra atención en cuanto a la violación de los derechos humanos no es el único país del mundo que requiere

autocráticos y dictatoriales en absoluto pero también merece nuestra atención también merece nuestra atención y nosotros de verdad y créame

me va a creer nos leemos el informe de amnistía internacional siempre en la parte que nos afecta

nos afecta igual que los informes de los relatores

unidas no voy a hablar por los demás y respecto a esa apelación que yo creo que no se ha hecho honor no tenía la intención que

qué pensarían los proponentes las proponentes con relación a si

lo mismo que pensamos con respecto a venezuela lo mismo nos ocupa y nos preocupa y recibimos

en españa nos ocupa nos preocupa y nos tiene también que incumbir cuando habla en este caso de venezuela insisto de verdad a los que no han compartido la enmienda transaccional que hay

conseguido y que sí puede ser cierto otros países también merecerían una proposición de ley para

y aquí también pero a eso nos dedicamos nos encontraremos cuando presentemos unos y otras esas proposiciones

que a nosotras nos han encontrado casi siempre gracias eskerrik asko

señor martínez zatón el pnv siempre siempre ha condenado y criticado los golpes de estado contra la democracia el franquismo

no le voy a decir donde estaba yo en aquel momento pero estuve siguiendo la crisis o los acontecimientos muy de cerca aunque fuera a dos mil km de distancia y también

en febrero del año mil novecientos noventa y dos donde por cierto también murió otro ciudadano vasco

de pura cepa en cuanto

que son delincuentes comunes jon goikoetxea leopoldo lópez ledesma qué son mesedez y cuando

la situación económica de venezuela está como está mire cuando el presidente hugo chávez llegó al poder

después de la elecciones que ganó democráticamente en el año noventa y ocho

a ciento cuarenta y seis dólares tuvo todo el dinero del mundo para arreglar los problemas estructurales de venezuela y no hizo nada y si usted dice hoy en día que la gente no puede votar bueno que puede votar perdón que hay millónes de ciudadanos que pueden votar es falso

no tienen papeles sino que cantidad de ellos no están ni censados váyase a los ranchitos de caracas váyase a petare donde por cierto se organiza el contrabando de alimentos desde petare

y son varios controlados por las células bolivarianas barkatu esatea eta guk ere

que justifica el uso de armas de fuego contra manifestantes y que eso mismo contradice expresamente la constitución nacional de

la oea o el parlamento europeo han realizado numerosos llamamientos al diálogo

y los compromisos internacionales de venezuela en materia de derechos humanos eso quiere decir que no hay democracia hoy en día en venezuela

no las convoco simplemente estamos todos esperando

pedir amparo a la mesa por las injurias y las acusaciones

del partido popular le pido a la mesa que

sobre la acusación a la financiación ilegal del partido de mis compañeros de podemos porque

que obliga al señor barrio a retirar esas palabras porque no hay ninguna

judicial que no sea esa policía política que tenía el pp en madrid

entiendo que el señor barrio mantiene las palabras por tanto mantiene las injurias y que la mesa no se pronuncia ante esto y volveremos a pedir amparo a la mesa en su próxima reunión

gonzález del partido popular el que le ha vendido el material antidisturbio a la policía venezolana es su gobierno y el gobierno

a ver quién tiene más relaciones con el gobierno de venezuela a ver quién tiene más igual que decenas de policías venezolanos están presos por abusos

exactamente igual y eso va por todos exactamente igual totalmente de acuerdo y volviendo a la proposición con las propuestas de euskal herria bildu en cuanto al fomento de la paz y el fomento al diálogo que es a lo que hemos venido y a lo que va nuestra intervención y evidentemente que consideramos que leopoldo lópez no es un preso político es un líder que alentó manifestaciones hay una frase y lo han quitado curiosamente de la proposición dijo año dos mil siete a manifestar por medios no pacíficos palabras textuales hay vídeos y seguramente los conocen en las en las manifestaciones que hubo en las universidades de venezuela las universidades privadas

y la operación la salida causó cuarenta y tres muertos como bien conocerá seguramente el señor aguirre y sí soy yo yo soy el primero que soy crítico con el gobierno con no haber cambiado la matriz petrolera la matriz de la economía petrolera durante los años en los que se pudo hacer

pero eso no justifica intervenciones extranjeras no justifica declaraciones de este tipo

primero que condena y al que no le gustan los antidisturbios ni aquí ni en ningún sitio no me gustan pero

coches policiales ardiendo esto es una oposición democrática manifestándose no

hay oposición democrática claro que sí pero no es esta que se está manifestando por medios violentos esa no es la oposición democrática y por eso y ahí iba mi intervención inicial lo que queríamos hacer y

ha reclamado y lo vuelvo a hacer solidaridad con todas las víctimas sin distinción con todas pero en los demás se han mezclado

a favor porque lo que estábamos proponiendo desde nuestro grupo en la intervención era uno fomento del diálogo nacional a través del mecanismo de

la intervención del papa y de los ex presidentes que hemos mencionado

en venezuela respeto a todas tres respeto a las decisiones de los poderes públicos de venezuela y cuatro respeto a la asamblea constituyente que se va a lanzar en estos momentos que se va a elegir por voto

ganen las fuerzas que apoyen el gobierno pierdan las fuerzas que apoyen el gobierno respeto a las decisiones que tome el pueblo de

a lo que nos tenemos que dedicar y no a este tipo de declaraciones que lo único que hacen es echar leña al fuego señor barrio le emplazo de nuevo a que retire sus palabras porque si no presente una denuncia si tiene pruebas de la financiación ilegal del partido político de mis compañeros